señora uriarte aprovechando usted el viaje de la lomce una vez más esta vez aprovechándolo porque no le obliga

pretende dar lo está preparando en su decreto de aplicación de bachillerato a la comunidad un trato de favor a la religión un trato de favor que no había tenido nunca en esta comunidad

entonces me puede decir cuáles son las razones que llevan a sus departamento

en el decreto de bachillerato que está usted preparando en detrimento de otras asignaturas más académicas léase

en detrimentos de otras asignaturas que van a necesitar los alumnos incluso

para poder hacer las pruebas específicas que las facultades van a recabar en competencia de todos eskerrik asko

desde el respeto a la máxima autonomía de los centros educativos y serán estos quienes organizarán su oferta seleccionando de este listado de materias las que crean más convenientes para su alumnado en dicha oferta de asignaturas se incluye la materia de religión y no la asignatura de religión católica

con las que el estado español ha suscrito acuerdos de cooperación es decir la religión católica la evangélica

con lo cual la religión católica recibe el mismo trato que las demás religiones en ningún caso
ha sido favorecida ni perjudicada en el borrador de decreto al que se refiere eskerrik asko uriarte andrea celaá andrea zurea da hitza

en este capítulo de declaraciones contradictorias del que antes le advertían

le hemos oído también decir que efectivamente usted oferta pide a los centros que oferten de manera obligatoria en segundo de bachillerato la religión por la sentencia

porque la sentencia como usted sabe del supremo desestimó parcialmente este y

por advertencia no sea que después me lo diga en la réplica usted pide aprovechando el viaje de la lomce que los centros nada menos que oferten

de manera obligatoria oferten dos horas de religión en primero de bup en primero de bachillerato y dos horas de religión en segundo de bachillerato a lo cual sí sí lo tiene usted

de asignaturas o de materias específicas la oferta según usted la tiene planeada va a ser obligatoria para los centros de bachillerato tanto en primero

y eso si que es un acuerdo estricto entre el estado español y la santa sede nunca el curso de orientación universitaria equivalente al segundo de bachillerato hoy ha estado ha tenido oferta obligatoria de los centros de la religión por motivos evidente por lo tanto

usted no tiene por qué incluir dentro de ese listado en las ofertas obligatorias la religión en segundo de bachillerato primera cuestión segunda cuestión no solamente hace esto oiga señora si no que además establece como un horario de referencia de cuatro horas y un horario mínimo de dos horas

requiere que si el alumno elije lo cual tiene bastante de una manera bastante inclinada a favor a elegir religión

centros educativos dos marías para completar cuatro horas que sería la equiparable a las opciones de cuatro horas más fuertes y todo esto

en el que el alumno se va a tener que enfrentar a pruebas no ya de selectividad si no pruebas de las facultades mire usted pruebas competitivas en libre concurrencia de las facultades mire usted usted está dando un trato de favor a la religión al que ni le obliga los acuerdos con la santa sede ni al que le obliga

porque mire usted le voy a decir solo dos ejemplos castilla y león

asturias oferta una hora en primero de bachillerato y ninguna

señora celaá está bien utilizar la información de forma parcial e interesada es decir lo que el gobierno pretende en este borrador que está elaborando

decreto de currículo de bachiller es que la religión se pueda ofertar en primero o en segundo de bachiller no en los dos

o prefiere ofertarlo en segundo y es el horario mínimo dos horas

es la religión y se deja a la elección del propio centro porque

pueda tener encaje lo podrá hacer pero es en uno o en otro no diga que hemos puesto más

por lo tanto no mezclemos no liemos más para que la gente diga no que es lo que se dice no señora no el mínimo

eso es otra y después es usted la que avanza las revalidas las pruebas de los centros de las facultades todo está en el aire señora todavía todo está en el aire no amenace

nabaria da ez gatozela bat irizpideetan porque el fondo de la pregunta que hoy formula parte de una premisa que no comparto con usted

como es el caso de leiza la necesidad de una profunda reflexión sobre el modelo policial que tenemos

supone no querer ver o no aceptar una realidad que ya existe un debate que ya existe puesto que ya estamos en ello el debate lleva tiempo sobre la mesa

de seguridad como en la academia vasca de policía y emergencias en el plan vasco de seguridad pública en este mismo parlamento y en la propia

estratégico es un debate dinámico constructivo no exento de dificultades

de cambio y de mejora cambio y mejora continua hacia un modelo de policía integral la policía que euskadi necesita en el entramado de seguridad pública que queremos para nuestro bienestar personal y para nuestro bienestar colectivo

no sé qué dirán sus estadísticas las encuestas que ustedes suelen manejar pero enumerando todos esos hechos todos esos acontecimientos los del pasado los del presente y como no se tomen medidas los que van a venir en el futuro como no pongamos solución a esto

no va bien de que este no es el modelo policial que precisa este pueblo

mejorado por el plan horizonte dos mil dieciséis

esto quiere decir que tampoco pueden asegurar pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos y la respuesta era

pueden asegurar la seguridad de los ciudadanos y no es una opinión es algo que podemos ver en el hecho que impulsa pregunta ustedes nos hablan de una policía integral yo le digo que para eso hace falta un debate una reflexión igualmente integral en eso nos vamos a determinar eh bildu y para eso pondremos los medios y los mecanismos adecuados

a las necesidades actuales y también a las necesidades futuras de la seguridad pública en euskadi la ertzaintza cuenta hoy con una estructura organizativa nueva radicalmente diferente a la que existía hace dos años la formación de las nuevas promociones responde a los retos que tenemos que afrontar actualmente

la comunicación con la ciudadanía está en una transformación permanente y algunos de los retos de seguridad a los que nos enfrentamos son absolutamente diferentes

pero los cambios se materializan a partir de las realidades existentes en el día a día paso a paso claro que se puede debatir el modelo policial pero no para empezar de cero como ustedes pretenden no para diseñar el modelo policial que mejor se acomode a la desobediencia civil que a usted le conviene o a la

hace un rato usted señor arzuaga ha tenido ocasión de conocer de primera manos los objetivos de cambio y transformación que plantea el plan estratégico

dos mil dieciséis y sabe que lo primero que impulsó este departamento fue la reflexión sobre el nuevo modelo policial en el propio seno de la ertzaintza

implantación y aplicación de este nuevo modelo de la

muchos esfuerzos materiales y humanos y esta es la realidad de los mecanismos de participación del debate y de la contribución que siempre han estado

es decir tenemos un modelo policial nuevo ya tenemos ya un nuevo modelo policial y esta es la realidad donde no hay lugar un modelo de sociedad sin policía donde no tiene cabida modelos policiales que pretenden ajustarse a intereses particulares como le digo
tenemos ya un nuevo modelo policial tenemos que seguir consolidándolo eskerrik asko eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta señora consejera se lo han preguntado antes ya otro parlamentario la izquierda

es decir los servicios auxiliares de eta es decir los que están al servicio de esa banda terrorista han convocado para mañana mismo contra la guardia civil en oñate esto nos parece absolutamente inaceptable inadmisible un acto de odio que pretende insultar y humillar a la guardia civil y a los familiares de los guardias civiles niños y niñas incluidos

no es algo nuevo es decir llueve sobre mojado actos semejantes se han llevado a cabo en ocasiones anteriores

que no pueda llevarse a cabo están ustedes a tiempo

indigno y vejatorio contra la guardia civil la institución que más ha luchado contra eta durante largos años ya ha respondido usted

ese acto suyo también lo consideramos absolutamente indigno eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren

no voy a entrar en su provocación señor maneiro como he contestado antes la

de deba urola el pasado día catorce de mayor recibió una comunicación de una manifestación para el día trece de junio

la comunicación recoge como es preceptivo en estos casos el motivo de la convocatoria el recorrido previsto el horario de la celebración el lema de la pancarta

se han analizado en detalle la comunicación todos los detalles de la manifestación que

podemos hacer como he dicho antes todo tipo de consideraciones podemos hacer consideraciones semánticas

estéticas pero lo de mañana señor maneiro en oñati

de la pregunta ni existen motivos fundados para

porque no hay un ataque real a la integridad moral de personas concretas y en segundo lugar porque tampoco lleva justificada

o una injerencia injustificada en la privacidad

en su comunicación el organizador que se responsabiliza de la convocatoria no ha planteado nada que pueda inducir a cometer actos delictivos o pueda suponer

a la reunión pacífica y sin armas está amparada por el artículo veintiuno de la constitución y se aplica conforme a lo dispuesto en la ley orgánica nueve barra ochenta y tres

sí señora consejera solo falta que usted añada que va

todos son parabienes le parece un acto defendible le parece un acto presentable

al menos la pena criticarlo denunciarlo denunciar ese acto promovido por los representantes políticos de eta por los auxiliares de eta

usted no va a decir nada en contra de ese acto por cierto cuál es la provocación cuál es la provocación defender a las víctimas del terrorismo es provocar defender

ni siquiera puedo plantear yo esta pregunta de por qué el gobierno vasco no impide ese acto humillante y vejatorio contra la guardia civil ni siquiera se puede preguntar esto en este parlamento dónde está la provocación el lehendakari pidió perdón

a las víctimas del terrorismo por no haberlas atendido como merecen durante años covite que es el principal colectivo de víctimas ha pedido que se impida ese acto

pasados los años pedirán perdón dentro de unos años por permitir este tipo de actos absolutamente inaceptables organizan un acto para insultar a la guardia civil

lo único que tiene que decir es que en fin no hay motivos fundados para impedirlo

es un acto convocado para insultar para humillar

a un determinado colectivo a sus familias niños y niñas incluidos

doscientos treinta a mí me da la sensación de que ustedes carecen de sensibilidad doscientos treinta guardias civiles asesinados por eta durante largos años la institución que más ha luchado contra eta durante todo este tiempo

vayamos a decir que es un acto inaceptable tienen que ustedes que impedirlo esto es lo que nosotros pedimos piden perdón pero en fin son solo palabras y encima nos acusa a los parlamentarios que preguntamos sobre la cuestión de demagogia no es demagogia es decencia es simplemente decencia

y pura demagogia nos parece absolutamente inaceptable están ustedes a tiempo no vengan luego a pedir perdón impidan ese acto ese insulto esa humillación que pretende organizar la izquierda abertzale los servicios auxiliares de eta contra la guardia civil

señor maneiro mire podríamos estar de acuerdo como he dicho antes en que determinadas cosas que rodean la convocatoria son de dudoso gusto y oportunidad política
que no es la mejor manera tampoco de contribuir a la solución democrática de reivindicaciones políticas

vídeo promocional incitan a un determinado posicionamiento político

actitudes más que dudosas en el tratamiento que dan a las personas que trabajan por la seguridad pública también es plenamente criticable que en ese vídeo

pero esas coincidencias de criterio o de opinión por mayoritarias que puedan ser no justificarían que prohibiéramos preventivamente el acto de mañana

a la vista de la comunicación que se ha presentado la persona que se responsabiliza de su organización y repito lo que he dicho antes no hay manera de estimar razonadamente

de que la convocatoria pueda ser constitutiva de delito y que como tal potencialmente generadora de alteraciones de orden público con peligro para las personas o bienes y esto es lo que literalmente dice la ley el artículo diez de la ley

que regula el derecho de reunión por lo tanto insisto lo he dicho antes

como lo viene haciendo en otros casos de manifestaciones o reuniones de similares características que básicamente es lo que nos ha pedido de forma excepcional

que se adopten las medidas que estimemos oportunas en torno a los hechos que pudieran producirse mañana en oñati dando cuenta del resultado a la fiscalía esté usted seguro que como siempre lo ha hecho la ertzaintza lo hará

se han dado casos de sustituciones en que no se haya respetado el perfil lingüístico

en alguna categoría profesional generalmente por periodos cortos y la mayoría de las veces en periodos vacacionales pero usted también sabe que

y en especialidades concretas fundamentalmente pediatría en todos los momentos del año no se dispone de profesionales que cumplan el perfil lingüístico requerido

en la justificación de su interpelación y leo textualmente en los centros de salud donde se respetan

y de la plantilla y se ofrece un servicio sanitario de calidad hace usted un reconocimiento explícito de nuestro respeto de manera general de los derechos lingüísticos

la justificación de su interpelación somos conscientes de que este es un problema parcial y pequeño

por un problema que considera pequeño y además con anticipación porque no hemos iniciado todavía la mayoría de las sustituciones del periodo vacacional estival me está usted como dirían poniendo la venda

o si lo prefiere practica usted en la línea de nuestro plan de salud medicina preventiva

con la justificación de la interpelación que afirma que de forma general en osakidetza

especialmente cuando se trata de servicios en euskera le voy a recordar algunas cuestiones que este mismo lunes expuse en la comisión de salud como el notable avance producido en estos últimos años en especial en el curso de esta legislatura

y al progresivo uso de documentos bilingües en todas las áreas asistenciales en el año dos mil cinco tan solo el siete coma siete por ciento de los y las profesionales

hoy en día el veintisiete coma cinco por ciento de los mismos son capaces de desarrollar su trabajo en euskera

la calidad de la asistencia que prestamos a los y las euskaldunes por supuesto que no nos conformamos ya lo hemos reconocido pero es un dato objetivo se ha multiplicado por cuatro el número de profesionales que cuentan con perfil lingüístico acreditado desde dos mil cinco

este progreso refrenda el interés y el compromiso del gobierno vasco con el euskera como parte esencial de la calidad del servicio sanitario aurrerapen

vencida lo cual no han sido sino situaciones puntuales y duración limitada en la mayoría de los casos porque precisaba una respuesta con carácter inmediato o porque no había profesionales con el perfil acreditado osakidetza está llevando a cabo un control sobre estas situaciones

justificación de todos los casos que se producen el compromiso firme e inequívoco con el euskera y su uso como lengua de servicio de trabajo

en el segundo plan de normalización del uso del euskera y su grado

lo que ha permitido poner en marcha medidas para intentar garantizar que no se lleven a cabo

preceptivo como ya le he dicho en muchas ocasiones el segundo plan de normalización del uso del euskera constituye la hoja de ruta que nos hemos marcado que no es otra que garantizar e impulsar el uso en osakidetza

y trabajadoras estamos realizando análisis de control de las contrataciones realizadas los datos obtenidos del último análisis realizado permiten concluir que del total de las contrataciones

se cumplió el requisito es decir se contrató a personal bilingüe en el ochenta y cuatro por ciento de las contrataciones en la mayoría de los casos del otro dieciséis por ciento

para sustituciones que debían llevarse a cabo sin dilación con el fin de no desatender el servicio existencial hala ere osakidetzak ematen duen zerbitzu

hizkuntza eskakizunei erreparatzen ezinbesteko zerbitzuak dira eta epe motzeko kontratazioak analizados los motivos de las contrataciones formalizadas a profesionales sin perfil acreditado se observa que

falta de profesionales bilingües en las listas propias de cada organización el segundo motivo fue la necesidad como requisito de disponer de conocimientos específicos

y para determinados puestos a este respecto hay puestos en los que además de la titulación resulta indispensable una espertizaje previo de las tareas a realizar también en ocasiones

destinos en zonas rurales o alejadas y en periodos estivales ha habido casos de profesionales que reúsan el desplazamiento renunciando al contrato

le diré vamos a realizar mejoras en los procesos de contratación a través de una instrucción de la dirección de recursos humanos para que en el momento de llamar a los candidatos para contratos de sustitución se disponga siempre del requisito del euskera de cada plaza se va a facilitar al personal que gestiona las contrataciones en los horarios

muchas veces en los centros que trabajan a turnos hay contratos que se realizan a última hora de la tarde fines de semana y festivos se les va a dar pautas precisas y listados actualizados por categoría estamos estudiando mecanismos para que de manera ordinaria la aplicación de contratación

no permita la mecanización por parte de los centros

lingüístico acreditado en plazas de euskera preceptivo y que sea obligatorio trasladar la necesidad y su justificación a la dirección de recursos humanos estamos acelerando el proceso de acreditación del perfil lingüístico segundo al colectivo de pediatras y médicos de familia que tienen el perfil lingüístico primero acreditado y se ha iniciado en enero de este año

específico además vamos a trasladar la normativa de los contratos de sustitución

en los contratos eventuales en los mismos porcentajes

el plan de euskera en la próxima actualización del acuerdo de contratación se va a proponer la posibilidad de acceder a las listas de contratación de otras organizaciones de servicios

candidatos disponibles con perfil lingüístico acreditado para cubrir sustituciones

vencida dicha actualización la someteremos a negociación como hemos sometido también el segundo plan

con todo ello esperamos minimizar el problema por el que me está interpelando hoy y que comparto con usted eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

sabe usted perfectamente que compartimos el objetivo a nosotros nos gustaría tener la euskaldunizacion de osakidetza más avanzada de lo que está el tamaño

el número de profesionales con una edad por encima de cuarenta y cinco años y la compartimentación que tenemos de especialidades centros y diversas circunstancias hacen

usted conoce perfectamente como esta legislatura fue un compromiso desde el mismo momento en el que presentamos nuestros objetivos en la comisión de salud

el primer año de la legislatura antes de finalizar el primer año aprobamos el segundo plan de normalización del uso del euskera lo tomamos como una de las primeras tareas

como es contratación temporal y contratación eventual no es que ni hayan ido a la mesa sectorial el día

llevan en la mesa sectorial desde el principio y como también sabe usted no todos los sindicatos tienen la misma posición

de disenso entre la mesa y osakidetza muchas veces esto afecta también a aspectos donde deberíamos ponernos de acuerdo

que con independencia de que no fuéramos capaces o no estemos siendo capaces de renovar el acuerdo global de condiciones laborales de trabajo de osakidetza hay determinados aspectos como la movilidad el plan de euskaldunización

en contratación temporal que son distintos a la normativa que traíamos desde atrás podían ser susceptibles

ni siquiera necesitábamos mayoría en la mesa sino estábamos dispuestos a acuerdos parciales con cualquiera de los sindicatos que quisiera y no ha sido posible vamos a continuar intentándolo desde luego tenga usted presente que todas las actuaciones llevadas a cabo por parte de osakidetza van a estar enmarcadas en el segundo plan

del euskera a veces estamos cambiando y aplicando sin acuerdo sindical pero interpretando

y vamos a intentar continuando asegurando la oferta de servicios bilingües

y de mejora de calidad en los servicios asistenciales porque para nosotros el atender

mejorar la calidad de las asistencia la instrucción de la que le he hablado estará aprobada

con esa idea trabajamos y probablemente como usted también conoce

en un periodo muy breve una acreditación de perfiles lingüísticos

previamente que también hemos tratado de negociar con parte de la mesa sectorial sabemos que es compartida por algunos sindicatos

a través de los medios de comunicación que lo han publicado y sin embargo no hemos sido capaces de que hubiera una firma detrás del acuerdo eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

podríamos hablar de contradicciones por eso hemos considerado que al realizar esta interpelación conseguiremos aclarar

que hoy en día nos preocupan y mucho y no solo a las personas que integramos este grupo parlamentario sino lo que es más importante a las personas que actualmente

las que sean podríamos empezar por ahí por las personas que

porque a día de hoy no manejamos una cifra ni siquiera aproximada beste aldetik eta gaian sakontzeko asmoz

bildu dela behin baino ez para nosotras ese comité es el foro apropiado para que tanto el colectivo de pacientes como el departamento de salud interrelacionen por una razón muy sencilla creemos que es el lugar adecuado para plantear casos concretos

que se puedan llegar a dar entre la estrategia y lo que los propios pacientes perciben ustedes se comprometieron a reunirse una vez al mes

una vez y nos apena que esa relación se haya retrasado o retardado y que no se cumplan los plazos acordados porque creemos que es el lugar correcto

idóneo para hacerlo en privado y con discreción también es casualidad que hayan pasado tres meses desde esa única reunión y justo hoy justo hoy convoque la siguiente para el próximo veintitrés de junio

otra cuestión que nos preocupa y que es confusa en torno a los nuevos tratamientos sobre el virus de la hepatitis cien

veinte millónes de euros en un año desde junio de dos mil catorce hasta hoy lo que no sabemos exactamente es la cantidad de dinero que se ha empleado

cuánto se ha gastado y de cuánto dinero se dispone para el segundo semestre del año porque llegados a este punto empezamos a pensar que lo que ocurre es que estamos ante un problema presupuestario y que esa equidad con la que según ustedes se va a tratar a los enfermos de hepatitis cien está supeditada a un límite presupuestario

así de claro y por eso echa balones fuera y no rebate punto por punto cada una de las cuestiones que se le plantean en torno a este tema eta benetako arazoa hori bada

lo que nos preocupa son los enfermos y enfermas y lo que nos apena

públicamente para contar su situación y en torno a ese tema uno de los aspectos más importantes nos parece que es la manera de priorizar y de administrar los medicamentos

eta berriro ere argitasun falta nabaritzen dugu cómo es posible que existan informes médicos donde el especialista asegure que los pacientes están pendientes de recibir el tratamiento de los nuevos

responda con una carta tipo una comunicación impersonal negando el tratamiento y aludiendo a que tienen que ordenar el acceso de los nuevos tratamientos a los pacientes

a usted no le parece que con esa contestación lo que están consiguiendo es crear malestar entre los propios pacientes guzti hau mahai gainean ipini eta gero

por enésima vez vuelve usted a preguntar qué intenciones tiene el gobierno vasco para tratar a los pacientes con hepatopatía crónica por el virus de la hepatitis cien

y por enésima vez se lo vuelvo a repetir estamos dando el tratamiento adecuado desde el punto de vista clínico para cada caso y eso no son intenciones son hechos

gabe me dice usted que le preocupan los pacientes y pues se lo agradezco comparto la preocupación a veces a uno le entran dudas si le preocupan a usted los pacientes o las multinacionales de la industria farmacéutica porque verdaderamente estamos ante un problema de salud y un ingente negocio

a alentarlo sabemos por supuesto y entendemos perfectamente que ante un problema de salud cualquier demora se hace larga

vaya por delante porque lo he dicho repetidas veces nuestro respeto y nuestro compromiso con quienes padecen esta o cualquier otra enfermedad pero se lo vuelvo a repetir no tenemos nada que ocultar ese comité de participación social que celebro que le guste se ha puesto por orden de este consejero incluso antes

la estrategia del estado los datos y los hechos están ahí y son la prueba más clara de lo que estamos haciendo

diferentes tratamientos algunos de ellos también bastante costosos pero sin duda

su posible aplicación a un colectivo numeroso de pacientes que estaban ahí acumulados

lo que ha significado un cambio sustancial y supone a día de hoy un reto sanitario un reto sanitario para euskadi que estamos abordando y que no vamos a dejar a nadie sin tratar y además vamos a intentar preservar también los derechos del conjunto de la sociedad vasca y de sus impuestos

farmacéutica multinacional mire me ha preguntado cuál es el presupuesto dedicado y lo hemos dicho por activa y por pasiva a los datos que les dimos a mayo llevábamos tratados más de setecientos pacientes

millónes de euros me ha oído también por activa y por pasiva cuando presente el proyecto de presupuestos en la comisión

que el presupuesto que estimamos fue de diez millónes de euros y me ha oído por activa y por pasiva que farmacia sería una partida ampliable y que no íbamos a dejar a nadie sin tratamiento por tanto

y claro lo que haga falta señora blanco lo que haga falta no vamos a dejar a nadie sin tratar pero evidentemente tampoco vamos a tratar aquellas personas que no necesiten el tratamiento de forma inmediata y no sean los casos

más graves porque no hay ninguna necesidad de tratar a día de hoy a día de hoy a todos los pacientes afectados por hepatitis cien no lo f cuatro f tres y f dos que marca la estrategia del estado sino y los f cero que también están infectados pero entenderá usted que una enfermedad que para tener una complicación mediana o grave o un grado de fibrosis hepática importante necesita

que tratemos a todos en tres meses pero ni hace falta ni es el objetivo y sobre todo que me lo habrá oído también decir sobre todo no todos

tienen capacidad de tratar una enfermedad compleja y grave la mayor parte de los especialistas de patología no habían utilizado

de segunda generación de estas características ninguno la mayoría

y no antes del uno de noviembre por lo tanto estamos trabajando con la eficacia los efectos secundarios de los ensayos clínicos

en muestras muy bien seleccionadas para intentar demostrar mucho más la eficacia

segundo como usted bien sabe a diferencia de la estrategia del conjunto del estado donde solo se están tratando

nosotros para favorecer la accesibilidad de los pacientes

y además en el hospital de san eloy en el hospital de mendaro en el hospital de bidasoa en el hospital de zumarraga y en el hospital de alto deba fíjese usted qué interés tenemos

que cada paciente durante el tratamiento de doce semanas tiene no menos de media docena de consultas y mire usted la hepatitis

importante pero en las consultas además hay enfermos de otras patologías que también merecen ser tratados además antes de iniciar el tratamiento necesitan una serie de pruebas diagnosticas y controles a través de una ecografía especial que se llama fibroscan que también

que una vez de acabado el tratamiento continúa con consultas frecuentes porque vuelve a pasar que hay pacientes que vuelven a tener carga viral entonces si lo quiere entender

no estará en mi mano no estamos ante un reto exclusivamente económico estamos ante un reto sanitario

no nueva pero tampoco muy antigua el primer diagnóstico es del año mil novecientos noventa señora blanco mil novecientos noventa con una bolsa de pacientes acumulada

pues aparecen en el mercado una serie de antivirales que por otro lado no tenga usted ninguna duda verá cómo se aprueban nuevos antivirales el año que viene y segundamente en el segundo semestre de este año de la misma eficacia y probablemente al aumentar la competencia

estamos abordándolo con responsabilidad la que yo le pido a usted si es que tanto le preocupa los pacientes la que yo le pido a usted

si a usted le parece falta de responsabilidad venir a interpelarle por un tema como digo como digo que se contradice enormemente entre lo que dice los pacientes y dice usted si a usted eso le parece

control parlamentario y yo le tengo que interpelar y usted responderá sin más lo que nos parece es que ustedes

es curioso que cuando el conflicto se mediatiza inmediatamente después el gobierno actúe parece que ustedes tienen que ir apagando fuegos constantemente

eso responde a una falta de planificación o una falta de presupuesto una de las dos cosas es curioso que en el pleno de control del treinta y uno de mayo este grupo le hiciese una pregunta muy concreta sobre tres fármacos

se ofenda por la pregunta negando la mayor y después sepamos que efectivamente ese medicamento se empezó a dispensar el uno de junio

es curioso como le he dicho en el primer turno que esa reunión del comité social y participación ciudadana que yo no he dicho quién la ha formado y me parece estupenda y la compartimos y celebramos que

ese comité lo que no compartimos es que ustedes se comprometan en esa reunión a celebrar mensualmente y luego no lo hagan curioso también

se les convoca para el veintitrés de junio de nuevo acción reacción y ahora

ataque como mejor defensa acción reacción mire estamos ya un poco cansadas

de ir en favor de las empresas farmacéuticas nada más lejos pensaba que lo iba a utilizar usted en el segundo turno pero veo que la ha utilizado en el primero aquí hay una cuestión muy clara

para nosotras es una pena que el que una persona viva o no dependa de cuatro de tres o de cinco grandes laboratorios que además se están

a costa de la grave situación de estas personas espero que esta vez

cuál es nuestra posición el presupuesto nos dice veinte millónes desde el año pasado sí diez millónes para este vale

son datos que no tenemos cuánto van a ampliarla el que sea necesario según qué criterios diez millónes más veinte millónes más cinco millónes más

se lo vuelvo a repetir se lo he dicho antes en el primer turno pero creo que no tenía el itzulpen zerbitzua y no me ha escuchado hemos tendido la mano como lo hicimos en la comisión

en esto porque creemos que es importante y porque además va a ser por el beneficio de los pacientes y estamos dispuestos a colaborar en todo lo posible para que esta situación mejore

precisamente para aclararnos lo que a mí y a nuestro grupo todavía no se nos ha aclarado porque sino eh bildu utilizará la misma estrategia que utiliza usted acción

nuestra reacción será una moción para registrarla en el pleno

señora blanco le agradezco la mano para tratar los pacientes de hepatitis cien creo que ellos también agradecerán que no se la coja mire

hoy después de retirar la proposición no de ley que tenía previsto para el jueves cuatro de junio cambiándola porque considero que era

absolutamente incongruente donde se hablaba de la industria farmacéutica y ha venido a volver a preguntar los mismo para hacer un pseudodiscurso diferente y no me diga que depende de lo que yo ahí ha venido usted efectivamente a eso

salta a la vista en cualquier caso allá cada cual con su responsabilidad

del comité de participación social no fue esa la primera reunión que ha habido entre el departamento y las asociaciones de hepatitis

ha habido más esa ha sido la primera reunión después de la orden del consejero de formar un comité de participación social

han preferido otros medios de agitación en vez de la relación directa con el departamento entenderá usted

donde mucha de la gente o una parte de la gente no tiene ninguna titulación sanitaria

sitio para sacar casos individuales y hacer evaluaciones clínicas por lo menos que no se haga ahí la mía el día que tenga una enfermedad

para las personas afectadas y también velando por el resto de personas que utilizan el sistema sanitario público y que están afectadas por otras enfermedades mire se conoce perfectamente cuál es el número de personas que pueden estar afectadas por hepatitis cien porque para eso está la literatura científica

no vamos a tener la suerte de ser distintos que poblaciones similares a las nuestras entonces no tiene que oír usted más que la literatura científica y coger la población y la prevalencia

etcétera probablemente el sur de europa tenga una prevalencia algo mayor pero probablemente nuestra prevalencia se parezca más al norte en cualquier caso son cifras que se pueden estimar bastante bien por lo tanto vuelvo a repetirle a ver si le queda claro va a quedar alguien sin tratar por un motivo económico que no señora blanco que no que yo no sé cuánto van a valer los tratamientos el pasado mes de noviembre

algo muy distinto a lo que pagamos entre junio y noviembre del año pasado estamos pagando muy distinto también a lo que se pagó entre noviembre y enero y estamos pagando distinto también lo que pagamos entre enero y mayo y probablemente si surgen nuevos fármacos también los precios

bienvenida a eso sí le podemos convocar nosotros no la tenemos pero no vamos a dejar a nadie sin tratar

a uno de junio del dos mil catorce pacientes con los nuevos medicamentos esta es nuestra verdad estos son los datos vamos a ir tratando

clínica nosotros no tenga dudas trabajamos para la sociedad vasca pensando en su salud y en su sistema sanitario y desde luego vamos a no intentar favorecer de ninguna forma los intereses de las multinacionales farmacéuticas

vamos a tratar a todos los pacientes señora blanco osakidetzak beti eskaini ditu

sí señor consejero ya llevamos más de dos años constatando la existencia de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas fuera de los establecimientos comerciales que están afectando al colectivo de personas mayores que en muchas ocasiones viven solas en sus hogares

y esto les hace mucho más vulnerables ante este tipo de prácticas comerciales engañosas pero no son las únicas personas afectadas kontsumobide ya elaboró un informe del estudio de ventas fuera de establecimientos comerciales a finales del dos mil trece

que prácticamente el cien por ciento de las personas mayores encuestadas les habían ofrecido estos productos fuera del establecimiento comercial en más de una ocasión

reconocía haber tenido conocimiento de esta cuestión y

algunos consejos básicos en este sentido los socialistas realizamos preguntas al pleno de control al diecinueve de noviembre

y reconocía efectivamente que se estaban dando estas prácticas comerciales y que ya se habían recibido numerosas llamadas y reclamaciones al respecto el veinticinco de noviembre nuevamente kontsumobide a través de su blog vuelve a avisar de este tipo de prácticas

ser víctima de abusos pero señor consejero estas prácticas fraudulentas no se combaten únicamente con la publicación de avisos en la web es necesario que la información llegue a todas y cada una de las personas vulnerables de padecer

de venta en sus propios domicilios por ello los socialistas ya presentamos una proposición no de ley para afrontar esta problemática llegando a un acuerdo unánime de todos los grupos donde instábamos como usted bien sabe al gobierno vasco a que a través del kontsumobide y el colaboración con todos los ayuntamientos vascos tengan o no tengan se establezcan líneas de actuación conjunta en la prevención e información de posibles fraudes y engaños

a que se amplíen los canales de información para que las personas más vulnerables y que por cierto no tienen acceso a la red

no tengan que padecer este tipo de engaños y estén prevenidas y apercibidas de estas prácticas que se pueden abortar en colaboración por supuesto con los ayuntamientos que son la administración más cercana al ciudadano y hay que considerar herramientas tan útiles

y revistas municipales que entiendo que son complementarias a kontsumobide

en domicilios particulares de algunas zonas de euskadi y de manera le voy a decir así que lo hemos detectado en toda

denominado campaña informativa familiar una campaña comercial que esconde la venta de productos relacionados con el descanso y salud y que la gente está

con el departamento por eso le pregunto a ustedes qué actuaciones está tomando su departamento en relación con esta cuestión eskerrik asko

xede eta horrenbestez osotasunari begira esku hartzen du esta intervención integral se realiza por medio de sensibilización información previo al consumo a través de la gestión de reclamaciones que puedan recibirse posteriormente

el pasado año recoge entre sus objetivos principales la información ágil y eficaz orientada a las nuevas necesidades y tendencias en línea

elaborado por el comité técnico recoge expresamente la acción de mejorar la agilidad y eficiencia de la actuación

para ello se planteaba definir de acuerdo con eudel un sistema de colaboración en comunicación sobre las problemáticas de consumo

llevó a retrasar un encuentro que teníamos programado entre kontsumobide y eudel para reunirnos con los y las responsables municipales en materia de consumo

definir mejor el sistema de colaboración y fundamentalmente

o sospechas en materia de consumo como la que usted me ha referido en cualquier caso debo comunicarle que a partir de

volveremos a mandar la convocatoria de la reunión al objeto de que antes de comenzar

esta formal actuación contemplada por kontsumobide incluso con carácter previo

la intención de kontsumobide es ahondar en el abordaje del conjunto de situaciones de riesgo

especialmente cuando puedan afectar a las personas más vulnerables somos conscientes de que distintos ayuntamientos tienen activados ya diferentes sistemas de comunicación con vecinos y vecinas a través de mensajes de móvil whatsapp correo electrónico bandos municipales etcétera

una propuesta de creación de sinergias y aprovechamiento de las diferentes vías existentes

y en red así en el momento en que se detecte una posible comercialización engañosa cualquiera de las partes integrantes de la red

y posibilitar en el menor tiempo posible que la información llegue al mayor número de personas

kontsumobide como sabe viene comunicando con carácter inmediato y por las diferentes vías informaciones y de este tipo generada recientemente por la venta de colchones en domicilios de personas particulares y las recomendaciones al efecto

ha sido un claro ejemplo de ello y en esa línea vamos a seguir eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna sarasua anderea zurea da hitza sí desde el escaño

pero evidentemente esa alerta que ha conocido kontsumobide precisamente ha sido porque algunas personas que las hemos detectado me considero hemos avisado rápidamente para que se tomen acciones pertinentes pero nos hubiera gustado que en toda la comarca de ayala por ejemplo que ha sido

se hubieran emitido bandos desde los ayuntamientos informando en los portales de esta cuestión y así se evitaría

por lo tanto dejar esta reflexión eskerrik asko eskerrik asko

las oficinas municipales de consumo y los propios ayuntamientos también tienen capacidad para hacerlo y realmente ha coincidido

le agradecemos la comunicación con el periodo electoral y probablemente eso ha sido el motivo del retraso como ya le he dicho

y también como yo creo que usted conoce realmente han sido hasta donde nosotros sabemos no demasiadas las personas afectadas lo cual no suavice para que aunque hubiera solo un caso

izan ziren segunda idea los objetivos de la nueva estrategia vasca contra el cambio climático

ambiciosos haré dos apreciaciones que se incardinan en los apuntados por la unión europea a pesar de lo que usted dice

materializables incluso diría autoexigibles para una sociedad avanzada como la vasca tercera idea los sectores con mayor incidencia en el fenómeno de cambio climático son la industria y la energía como bien señala usted y también el transporte

la evolución de los sectores señalados es dispar por un lado

se encuentran en una afortunada curva descendente por razones diversas pero en cualquier caso con una conciencia cada día mayor y creciente en la sociedad y en el propio tejido industrial y empresarial vasco

es un fenómeno creemos irreversible el cambio en las fuentes productoras de energía

es también una constante en la que debemos seguir trabajando sin embargo

todo debe decirse el transporte constituye en términos de cambio climático una preocupación cada día mayor su incidencia es cada día más preocupante y de manera decidida debemos abordar un modelo de movilidad integral para su transformación radical si no queremos tener problemas a futuro aquí sí nos queda un trabajo ímprobo que estamos abordando y que esperamos dé resultados en un tiempo razonable

la estrategia climática del gobierno vasco es una estrategia abordada por el conjunto del gobierno de sus departamentos y que afecta de manera global y conjunta las diferentes políticas sectoriales

deben contemplar sus impactos en el fenómeno climático como exigencia de la estrategia definida no solo por el departamento de medio ambiente que también sino por todo el conjunto del gobierno

euskadi se ha fijado al año dos mil cincuenta el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un sesenta por ciento respecto al mil novecientos noventa eso es lo que dice el texto publicado de la estrategia vasca para la lucha contra el cambio climático luego en prensa ustedes salen diciendo que es un ochenta por ciento

en qué quedamos a quién quieren engañar y sobre todo por qué nos quieren engañar y claro que vamos a tener un monográfico porque euskal herria bildu lo ha pedido en este parlamento

ustedes venden humo y los trescientos sesenta y cuatro días restantes ustedes lo que hacen es

muchísimo humo usted ejerce un día de consejera de medio ambiente y los trescientos sesenta y cuatro días restantes es la señora tapia por ejemplo la que le dice

fósiles en este país llámele fracking

llámele como quiera y no porque lo dice euskal herria bildu

en su última radiografía social del medio ambiente para hego euskal herria usted un día es consejera de medio ambiente ese día el día internacional del medio ambiente y los trescientos sesenta y cuatro días restantes usted es la consejera del tav de ese medio de transporte

que ha emitido en las obras no se van a recuperar nunca y es mucho menos eficiente en emisiones que el autobús que une bilbo y donosti y usted

por lo tanto dejen de vender y emitir humo y den la cara con transparencia y díganos cuáles son los verdaderos datos a los que se van a comprometer ustedes o van a comprometer

para los próximos años traigan la estrategia al parlamento la verdadera estrategia la que venga con los datos y que diga exactamente cuáles son las reducciones que se van a hacer

y tenga como referencia el año mil novecientos noventa es decir treinta por ciento para el dos mil veinte cuarenta por ciento de reducción para el año dos mil treinta y ochenta por ciento de reducción para el año

de referencia y díganos sobre todo cómo lo van a hacer con qué medidas y con qué dinero eskerrik asko maeztu jauna oregi andrea

euskadi está comprometida con el cambio climático como decía antes desde hace muchos años no ahora desde hace muchos años desde el año dos mil ocho en el que se aprobó la primera estrategia estamos en la vanguardia de las regiones que están trabajando en esta materia

apela a los ciudadanos a las instituciones a la sociedad en su conjunto a las administraciones y por eso nosotros estamos hablando siempre de un ejercicio de responsabilidad compartida queremos buscar acuerdos queremos concertar y queremos trabajar a partir de esta estrategia que presentamos el día dos creo que fue el día dos de junio

ha habido documentos previos colgados en la web efectivamente y distribuidos en diferentes lugares y analizados y debatidos por el conjunto de instituciones sociedad asociaciones etcétera que han hecho sus aportaciones todo eso ha enriquecido el documento hay un documento definitivo en este momento

documento dinámico no es estático la estrategia de cambio climático debe seguir trabajándose y debe de seguir teniendo aportaciones y corrigiendo la senda por la que va porque estamos hablando a objetivos a dos mil cincuenta que no pueden en ningún caso ser estáticos